les presento una iniciativa que pretende modificar el apartado cuatro del artículo diecisiete de la ley de conservación de la naturaleza del país vasco

la propuesta que traemos a este pleno se hace eco del clamor que existe en álava contra el uso del fracking

tengo aquí anotado técnica de extracción por fractura hidráulica

pero entiendo que en esta cámara ya conocen ustedes lo que es el fracking porque ya han debatido otras iniciativas sobre este tema así que solo les robaré unos minutos de este pleno para situar la modificación hoy hablaremos tres voces distintas tres voces venidas

de las juntas generales de álava y venimos con una encomienda alavesa porque álava

euskaldun más amenazado ante la posibilidad del uso de esta técnica y donde antes se reaccionó desde el movimiento ciudadano ante el fracking

las tres voces que hoy hablamos en este punto del pleno del parlamento vasco proponemos que no pueda utilizarse la técnica del fracking ni para explorar

en los espacios naturales protegidos ante el listado de permisos que autorizaban el uso del fracking en territorio alavés la respuesta no se hizo esperar

que ha permitido alcanzar acuerdos plenarios en entidades locales declaraciones de espacios libres de fracking en el territorio alavés

legislativa popular o esta petición de mínimos

y es que los permisos que autorizó el gobierno afectaban al noventa por ciento del territorio alavés incluida la práctica totalidad de la red de espacios naturales protegidos al principio solo los partidos de izquierda cuestionábamos el uso del fracking basándonos en los principios de prevención y regresión

justificaban el apoyo exploratorio de esta técnica como un instrumento que permitiera conocer los recursos gasísticos del territorio sin embargo la realidad

está removiendo posiciones iniciales prueba de este movimiento es que estos días se debatirá en juntas

una moción del pnv y del partido popular en la que plantean la posición en contra de esta técnica al considerar que es nefasta para el medio ambiente aun más allende nuestras fronteras en la vecina cantabria el partido popular está pensando prohibir el fracking algo que podría ocurrir en la cámara cantabra en el mes de marzo y digo yo que si ambos partidos opinan que la técnica es perjudicial en bizkaia y en cantabria

que lo es en álava me atrevería a añadir que incluso el partido socialista ha escuchado el clamor contra el fracking y se habrá dado cuenta

en nuestro territorio podría tener un impacto medioambiental y económico

de consecuencias irreparables y aunque los partidos de izquierda hoy tenemos claro que rechazamos la técnica del fracking en cualquier parte en zonas protegidas y no protegidas

somos conscientes de que no es una petición de la izquierda la que traemos hoy sino el fruto de un acuerdo un acuerdo de mínimos que solo ampara a los espacios naturales protegidos y alcanzamos este acuerdo para modificar esta ley porque coincidimos en la necesidad de legislar

se ha demostrado que es insuficiente para proteger y garantizar derechos y se hace necesario legislar por eso proponemos esta modificación legal de la ley de la conservación de la naturaleza del país vasco centrándonos únicamente en el fracking

no sería extraño que ustedes en esta cámara fueran capaces de dar un paso más allá y tomaran en consideración admitir precisamente en esta cámara

porque como les he dicho esto que traemos hoy es un acuerdo de mínimos necesario
pero un acuerdo de mínimos gracias eskerrik asko

en este contexto en el que coinciden la intención de iniciar una técnica tan peligrosa como el fracking en un espacio en vías de ser declarado como parque natural

y la preocupación mostrada en actas oficiales por las empresas americanas socias del gobierno vasco en el desarrollo del proyecto

se presentó la iniciativa que hoy aquí defendemos esta iniciativa se registró el diecisiete de mayo de dos mil doce y desde entonces

llevada a comisión donde ningún grupo presentó enmiendas y se aprobó el dictamen

hoy nueve meses después tres representantes de las juntas generales de araba defendemos esta propuesta en este foro qué es lo que pide esta iniciativa establecer mediante la modificación del artículo diecisiete punto cuatro de la ley dieciséis barra mil novecientos noventa y cuatro

pero es evidente que las juntas generales no son la punta de lanza del movimiento contra el fracking en araba

y se ha plasmado en diferentes iniciativas este clamor social se palpa en araba

los veintisiete municipios que se han declarado libres de fracking la caricaturización de la inauguración de unas jornadas técnicas orquestadas para glorificar el fracking la manifestación de octubre una de las más numerosas de los últimos años en gasteiz donde trece mil personas gritaron alto y claro que no quieren el fracking

el pasado catorce de diciembre la juntas generales de araba con los votos a favor de ezker batua pse bildu y pnv

en la que instan a las instituciones vascas implicadas ustedes a que la medida de sus competencias prohíban cualquier proyecto de extracción de gas a través de la técnica del fracking y que incluyan su prohibición expresa en cuantas leyes sean necesarias

generales de araba así como la sociedad alavesa eso es lo que les pedimos

y esta propuesta la apoyan tres grupos con representación parlamentaria más que suficiente para sacar adelante cualquier modificación legal

en definitiva araba desde la calle y desde sus instituciones lo está expresando de manera muy clara

lo que no parece tan evidente es que todos los partidos políticos defiendan los mismos intereses en todos los lugares las juntas generales de araba están a menos de doscientos metros de aquí

como respuesta a un riesgo cierto pero es más que evidente que esos nueve meses transcurridos desde la presentación de la misma han dado para mucho

en ningún lugar cuáles son las decisiones que ustedes van a tomar al respecto

cómo se va a plasmar su posicionamiento de campaña electoral contra la exploración y explotación del fracking es evidente que las declaraciones de intenciones no son suficientes acerca

quiero hacer algún apunte ya que se ha puesto como excusa la tramitación de esta iniciativa de juntas generales es más que evidente que la iniciativa que hoy aquí defendemos y la que se ha presentado a través de una ilp

la otra propone una nueva regulación para los hidrocarburos no convencionales y la técnica del fracking en todo el ámbito de la comunidad autónoma se trata de iniciativas diferentes

porque los argumentos de la ilp podían incorporarse como enmiendas a esta iniciativa de juntas generales que ya está en marcha
y es que además según esas informaciones subyace casado jauna mesedez

según esas informaciones subyace la intención de no pretender duplicar procedimientos y eso es absolutamente falso cuál es el procedimiento por el cual quienes han impulsado esta iniciativa legislativa popular fracking ez araba pueden incorporar enmiendas a esta u otra modificación legal ninguno

que en las reuniones previas ninguno de los partidos puso sobre la mesa ningún problema para la tramitación de dicha iniciativa únicamente el pp comunicó que pediría informe jurídico y sin cumplir su palabra dio un voto contrario a la iniciativa la decisión tomada el martes de impedir la tramitación de la ilp

momentu honetan eskatzen duguna que ustedes asuman compromisos para dar solución a la clara voluntad de la sociedad alavesa que se legisle contra el fracking y tal y como se piden en la juntas generales se realicen cuantas modificaciones legales

prohibirlo y que permitan además que se pueda presentar una ilp que trate el tema

asuman como primer paso hacia objetivos mucho más ambiciosos la tramitación de esta iniciativa

no es habitual que las juntas generales lleguen a este parlamento pero el procedimiento para hacerlo tampoco es sencillo

modificación de la ley de conservación de la naturaleza para establecer la prohibición del fracking en los espacios naturales protegidos que nadie aproveche la ocasión para tramitar otras modificaciones legales

mediante otros procedimientos que exponga claramente sus posiciones no nos utilicen duela egun batzuk ingurumen sailburuaren adierazpenak entzun genituen frackingaren inguruan

bertan esaten dugu las juntas generales de álava en la actual situación y respondiendo al clamor social existente instan a las instituciones vascas implicadas a que en la medida de sus competencias prohíban cualquier proyecto de extracción de gas

y que incluyan su prohibición expresa en cuantas leyes sea necesaria lehen esan dudanez

fracking ustiapenetako planta bat estatu batuetan

manifestar su criterio favorable a la toma en consideración de la citada proposición de ley si bien se considera que la proposición de ley presentada por las juntas generales de álava en los términos en los que se formula contraviene la jurisprudencia del tribunal constitucional

de usos y actividades amparadas en la protección del medio ambiente eta norbaitek esan ahal du

buruz aldeko bozka egingo duela como ya se ha señalado

en la pasada legislatura tuvimos la oportunidad de debatir ampliamente en dos ocasiones sendas proposiciones de la ley de modificación de conservación de la naturaleza precisamente en ambas

sobre el artículo diecisiete de la ley el mismo que ahora resulta afectado por la propuesta

la primera de las modificaciones fue para introducir ex novo el punto cuatro en su actual relación y la segunda fue justamente para su modificación

también desde el respeto más absoluto a la propuesta realizada por las juntas generales de álava nuestro grupo

tiene que poseer una vocación de permanencia las leyes tienen que perdurar en el tiempo no podemos andar cambiando de criterio cada dos años señorías

entre otras cuestiones con la máxima información disponible a fin de

es imprescindible en primer lugar analizar la necesidad y oportunidad de la modificación

se debe también valorar si existen alternativas a la propuesta realizada si se pueden conseguir con los medios existentes

y sobre todo analizar las consecuencias jurídicas y económicas para los afectados bien sean particulares o bien sea la propia administración

lo que hoy aprobamos en esta cámara es la toma en consideración de la propuesta de modificación de la ley

sobre todos estos aspectos que usted ha comentado y desde luego que trabajaremos para conseguir la mejor regulación legal aquella que

los intereses públicos ambientales y los intereses públicos mineros existentes en estos ámbitos por eso vamos a votar a favor de esta proposición y como digo tiempo habrá en comisión de analizar todas estas cuestiones eskerrik asko

buenos días gracias señora presidenta señorías bienvenidos a esta cámara a los representantes de las juntas generales de álava gracias señores procuradores

tan atento como siempre a todo lo que acontece en la vida política y social de la comunidad autónoma y en especial de álava

el asunto de la proposición de ley que hoy nos han presentado los representantes de juntas generales de álava no es nuevo para esta cámara

la explotación minera con licencias administrativas que han sido declaradas nulas y además en zonas protegidas

afectada como iniciativas de los grupos presentes en la cámara sin conseguir paralizar estas prácticas abusivas hecho que llama la atención

a este hecho que nos está destruyendo parte del paisaje de la comunidad autónoma con todos los beneplácitos del gobierno el año dos mil diez se aprueba en esta cámara una modificación de la ley de la naturaleza que coincide en parte

que han propuesto en la proposición de ley los representantes de las juntas de álava en la que se pide la toma en consideración y dice dentro de los límites y zonas de afección de los espacios protegidos no podrá llevarse a cabo explotación minera alguna ni a cielo abierto

subterránea pero curiosamente hoy

iniciativa resulta que en esta cámara votó en contra quiero decir el grupo nacionalista vasco cuando esta cámara en el dos mil diez propuso esta modificación el partido nacionalista votó en contra y nos dijo

yo me remitiría a la intervención que hizo el partido nacionalista vasco en aquella toma de consideración que era una propuesta ilegal lo sorprendente es que sabiendo que es una propuesta ilegal el grupo nacionalista vasco en juntas generales de álava apruebe esta iniciativa

ustedes son responsables cuando se trae una iniciativa a una cámara lo primero que debe cumplir es que sea legal la iniciativa y sabiendo que no es legal la incorporan la traen como iniciativa a esta cámara como saben esta modificación fue recurrida por los afectados y el tribunal superior ha sentenciado

los usos prohibidos y permitidos dentro de los límites de los espacios naturales protegidos

instrumentos de ordenación y de uso y gestión los que decidan en última instancia la oportunidad o no de que dentro de sus limites se den actividades

subterráneas efectivamente cuando hicimos esta modificación no acertamos con la fórmula adecuada para conseguir el fin previsto que eran los abusos sistemáticos de extracción de canteras

el interés desde luego para el grupo popular no es otro que la utilización del patrimonio natural debe prevalecer la protección ambiental sobre la ordenación territorial urbanística

que siempre añadan ustedes la coletilla

porque ustedes detrás de su grupo también tienen intereses económicos tal vez

a nosotros en esta iniciativa no nos mueve ningún interés económico ni en ninguna que presentemos aquí será el interés económico de la sociedad pero desde luego

ya de una vez el utilizar esa coletilla que no tiene ningún fundamento y si tiene algún fundamento lo digan pero con nombre y apellido

no se puede decir esto sistemáticamente como les decía para el grupo popular la utilización del patrimonio natural debe prevalecer la protección ambiental sobre la ordenación territorial urbanística e intereses económicos

alegando diversos aspectos principalmente hacía referencia a que no era la fórmula idónea para resolver el conflicto de intereses que se

haciendo referencia a dos sentencias del tribunal constitucional sobre este aspecto y que vienen a decir que las comunidades autónomas no pueden establecer una prohibición general de las actividades mineras de las secciones cien y quinientos

zonas y referidas a las secciones a y b pero curiosamente

y que no corresponde para nada con el criterio que el mismo grupo puso de manifiesto en esta cámara la sentencia del tribunal supremo contraria a la modificación

está provocando recursos de los afectados y sentencias millónarias que merman las arcas del gobierno y engordan los bolsillos de los recurrentes

ahonda más si cabe en los argumentos que esgrime el tribunal superior para considerar

sería añadir más afectados a la lista de posibles recurrentes y si la técnica

volveremos a modificar la ley siempre hemos dicho y toda la cámara no se pueden hacer ad hoc hay que hacerlas con una capacidad suficiente para que sean de amplio efecto

ilegal lo que se propone y entendemos que es un mal precedente para esta cámara la toma en consideración de proposiciones de ley no ajustadas a derecho sobre las que la justicia ya ha dictado sentencia tampoco entendemos el acuerdo del gobierno de toma en consideración de esta iniciativa al que añade

del tribunal constitucional sobre la ilegalidad del establecimiento de prohibiciones de usos y actividades amparadas en la protección del medio ambiente entendemos

no es el mejor comienzo para este gobierno decir que aquí el gobierno ha expresado

con criterios bastantes subjetivos como por ejemplo inoportuna no coincide en el tiempo innecesaria la modificación pero si ya tenemos

no la considera legal no entendemos cómo se presenta o se toma en consideración algo así el portavoz del pnv ha empezado su intervención diciendo que vota a favor de la iniciativa

cuando intentamos tomar en consideración la modificación de ese artículo que es ilegal decía señoras cualquier observador que hoy nos esté escuchando esté siguiendo este debate

producido en este parlamento hace dos años con motivo de la modificación de la ley de conservación de la naturaleza es posible que termine con un enorme dolor de cabeza si intenta ya racionalidad en la política parlamentaria seguida en este asunto señor

explíqueme la racionalidad de su postura en juntas y en esta cámara para así usted no tendrá dolor de cabeza y los demás buscaremos los remedios señor aldaiturriaga la pregunta es cuando esta ponencia se abra qué van a proponer ustedes en la ponencia porque la ponencia aprobar este artículo va a durar medio minuto es decir es ilegal no se puede admitir entonces usted ha dicho que van a hacer enmiendas explíquenos

la dirección de su partido que es la dirección del gobierno porque creo que sería que se conozca en este debate queremos saber si su idea es modificar esta ley u otras leyes u otros planes sería interesante saber qué esconden detrás de su sí a esta toma en consideración

gracias presidenta y buenos días a todos en primer lugar dar la bienvenida a los representantes de las juntas generales de álava y a las personas que han querido a este debate en primer lugar decir que comparezco en este pleno en nombre de mi grupo parlamentario para exponer la posición de los socialistas vascos entorno a esta modificación de ley

hoy volveremos a plantear las mismas razones que hemos hecho durante la última legislatura como es lógico

manifestamos un respeto absoluto a lo que aquí traen las juntas generales de álava pero el respeto no está únicamente unido a darles la razón por el mero hecho de ser una institución

la primera que han querido eludir todos los grupos parlamentarios excepto el grupo parlamentario popular referida al artículo diecisiete de la ley dieciséis barra mil novecientos noventa y cuatro de treinta de junio de conservación de la naturaleza del país vasco y la otra

lo que nos ha quedado aquí claro es que una vez más se utiliza cualquier tipo de iniciativa

respecto a la primera decir que en el año dos mil diez con un amplio acuerdo de esta cámara

aprobamos la prohibición genérica tanto a cielo abierto como de forma subterránea de áridos en espacios protegidos

de la deriva que en muchas ocasiones se estaban llevando algunas explotaciones de canteras y desde luego los socialistas nos sonrojamos en decir que sí aquí queríamos tratar la problemática con el tema de la explotación de las canteras y sobre todo de algunas canteras y hoy igual que el primer día estamos de acuerdo con la filosofía y el contenido de aquel párrafo

y todos aquí sabemos que por mucho que el estatuto de autonomía nos confiera competencias en materia de medio ambiente una ley autonómica nunca puede contradecir una ley orgánica emanada del estado y con esta modificación de ley aprobada en el año dos mil diez se contraviene la ley de minas

el grupo parlamentario popular junto con los socialistas presentamos una iniciativa para intentar solventar los problemas que aquella primera iniciativa le estaba suponiendo a la administración

intentando proteger el medio ambiente de una forma más genérica desde las canteras se están produciendo recursos ante los tribunales reclamando responsabilidades patrimoniales y ante esta situación no debiéramos olvidar la sentencia del tribunal constitucional que en el año ochenta y ocho

que aquel día del dos mil diez aprobamos en esta cámara el grupo parlamentario socialista entiende que no debemos dar alas

se agarran a una modificación legal como esta para seguir engordando sus arcas a costa de la administración pública una administración que creo que hoy no está como para que vayamos regalando indemnizaciones haya por nueve millónes de euros algunas

aunque manifiesta inicialmente un criterio favorable a esta misma reconoce que contraviene la jurisprudencia del tribunal constitucional

en la protección del medio ambiente entendemos que con esto el gobierno del partido nacionalista vasco

que un poco presos por la votación del pnv en las juntas generales de álava puesto que el señor aldaiturriaga siempre ha defendido lo contrario en esta cámara esta es la primera razón por la que no podemos dar nuestro voto favorable a esta iniciativa si la legislatura pasada

porque reconocíamos las consecuencias económicas que esto estaba suponiendo e iba a suponer a la administración no entendemos por qué ahora intentamos de esta forma dar paso a algo que desde el inicio reconocemos que es ilega y sobre todo lo que no entendemos es la posición del pnv

de forma favorable a la toma en consideración porque entendía que había que solucionar el error que ya he dicho que habíamos cometido

a algunos grupos políticos es en torno a la prohibición

la modificación de la ley de conservación de la naturaleza nada tiene que ver con los yacimientos de gas ni con la extracción del mismo

y no compartimos mezclar dos temas en torno a una ley especifica que normativiza otros ámbitos entendemos como he dicho al comienzo que esto es una muletilla que se ha metido con calzador absolutamente en una ley que nada tiene que ver con el fracking los socialistas al principio buscamos la seguridad jurídica que permita garantizar la protección del medio ambiente y entendemos que no es favorable para este objetivo aunar asuntos polémicos que en principio no deberíamos de relacionar

en multitud de ocasiones en esta cámara y desde luego los socialistas no huiremos de este debate porque nunca hemos eludido hacerlo cuando llegue una iniciativa que hable

desde luego seguiremos manteniendo los criterios y desde luego esta portavoz nunca tendrá ningún problema como no lo ha tenido para debatir en cualquier foro y con cualquier portavoz como señor maeztu no eludimos debatir de modelo energético porque pero lo que tampoco

también debatiremos del modelo energético de euskadi cuando usted quiera pero lo que tampoco puede ser es que se aproveche cada tema entorno al medio ambiente

que bastante encendida está ya en euskadi y que acaba por extenderse al resto de españa por tanto este es el segundo

a favor de esta iniciativa se incluye un tema y una consideración que nada tiene que ver con la ley que se pretendía modificar pero independientemente de lo que en esta ocasión votemos los socialistas parece que saldrá adelante con los votos del partido nacionalista vasco y con los botos de eh bildu por tanto tendremos el tiempo suficiente para debatir aunque como a dicho la señora lópez de ocariz creo que esta ponencia durará una única sesión y yo también le quería preguntar al señor aldaiturriaga cuál es la posición del grupo nacionalista entorno

modificar porque creo saber cuál es la primera suposición respecto a la primera parte del párrafo

pero sí que me gustaría saber cuál es su posición respecto a la coletilla añadida que estaría bien saberlo en esta cámara y estaría bien que lo supieran todos lo que han querido venir a escuchar este debate y por todo esto señor maeztu y señoras y señores de eh bildu

es el debate de la técnica de fracking parece que ustedes

que por cierto hay que informarse bien no se votó viene de un informe jurídico de la cámara y una vez más los socialistas estamos de la mano de la ley también del reglamento interno de la cámara

por lo tanto el fracking no estaría debatido en esta cámara y por lo tanto el argumento base para

a que este debate pudiera sucederse por tanto

porque desde luego el grupo socialista llevó a la cámara una posición favorable con un informe jurídico

y profundizar en lo que tenga que ver con la técnica de extracción de gas

sino lo que se a dicho sí a intentar buscar una forma de progreso para esta comunidad autónoma y no dejar pasar oportunidades

socialista votará en contra de esta iniciativa por los siguientes motivos no podemos avalar una iniciativa

inconstitucional por lo tanto ilegal no pretendemos facilitar

mientras siguen destrozando el medio ambiente y los espacios protegidos muchas veces con algunos avales políticos

el fracking debe cumplir tres preceptos ineludibles e innegociables sin los cuales nunca apoyaremos el desarrollo de esta técnica ni de ninguna lo décimos hoy como lo décimos desde octubre del año dos mil diez que creo que es cuando empieza a tratarse este tema y no podemos apoyar esta iniciativa porque sería tanto como ir en contra de nuestra propia iniciativa

porque sería tanto como ir en contra de nuestro grupo juntero en las juntas generales de álava entendemos que eh bildu puede jugar a la irresponsabilidad al menos en esta cámara

y menos cuando se es y se va a ser responsable de la gestión de un proyecto no se puede dar un criterio favorable cuando se reconoce que es ilegal por tanto a partir de aquí

por modificar este texto legal en el trámite siguiente desde luego también intentando proteger el medio ambiente y también intentado proteger

señora lópez de ocariz señora rojo

que no se puede traer una propuesta que es ilegal denominándola ya ilegal la propuesta que hacen las juntas de álava cuando fue el partido popular quien trajo la propuesta de cambiar el artículo diecisiete de la ley de conservación de la naturaleza fue el partido popular que se quiso apuntar aquel tanto el que trajo

y fue el gobierno del partido socialista con todos los informes digo yo que favorables jurídicos de aquel gobierno quien tramitó aquel cambio para dos años después hacer una ciaboga terrible y querer cambiar ese artículo que sean ustedes los que vengan aquí a dar

y a defender su propuesta yo creo que esta fuera de lugar es que fueron ustedes los que cambiaron ese artículo que ahora dicen que es ilegal que para mí no lo es

que diga usted que en su partido no tiene intereses económicos y que nos diga que euskal herria bildu tiene los mismo o más intereses económicos el día que euskal herria bildu

y los sobres que recibe su partido igual podemos

en estos temas pero además me dice que diga con nombres y apellidos y le voy a decir jose maría aznar

de endesa de una empresa energética sé cuáles son los intereses que ustedes van a defender aquí y en otros lugares

van a defender aunque no tendría ningún problema en decir también que felipe gonzález es

ningún problema en decirlo eta gainera erabiltzen dituzuen

ingurumena babesteko argumentazioarekin debeku orokorrak jarri artículo ciento tres del texto refundido de la ley de aguas año dos mil uno el gobierno podrá prohibir en zonas concretas aquellas actividades y procesos industriales cuyos efluentes a pesar del tratamiento a que se han sometidos

de contaminación grave para las aguas hau da debeku orokor bat ere ingurumen

si nos posicionamos a favor de la toma en consideración

si nos posicionamos en su momento en contra de la toma en consideración del año dos mil diez

el grupo parlamentario mantenemos la coherencia sobre este asunto en esta cámara la absoluta coherencia ya se lo dijimos en el año

que lo que ustedes traían aquí era una chapuza técnica

pero es que además han creado ustedes un problema político de primer orden para nosotros no es necesario

de manera que no se preocupen que seguiremos manteniendo la coherencia en comisión sobre esta materia

y a la señora lópez de ocariz decirle que seguramente le seguiremos poniendo dolor de cabeza pero para resolver los problemas que preocupan a la ciudadanía en eso nos empeñaremos también por tanto como decía en mi primera intervención buscaremos la fórmula

todos los intereses públicos en juego en este tipo de situaciones besterik

sobres que hemos recibido los cargos públicos del partido popular son los sobres de sus asesinos esos sobres sí que hemos recibido

de respeto y a mí me puede decir y a toda la cámara y a toda la ciudadanía a esa que ustedes están representando cuánto dinero público y privado hay detrás de la pancarta que llevan ustedes fracking ez estaría bien que con la iniciativa presentasen esos datos también

los tribunales ni usted ni yo los tribunales los tribunales ni usted ni yo decidimos esto y si lo que aprobamos aquí es ilegal lo que estamos facilitando

en este caso el fracking por lo tanto señor maeztu creo que se mueven en un terreno

farragoso y con mucho barro solo por llevar

de mover a la masa a su masa y esa política

de fundamento señor maeztu nosotros

en muchas ocasiones en esta cámara porque hemos tenido ocasión de debatir sobre esta actividad en esta cámara y siempre hemos dicho que

y apoyaremos aquellas exploraciones pero primeramente tienen que cumplir y tienen que tener plenas garantías de preservación del medio

tenemos por delante la preservación del medio ambiente y detrás los intereses urbanísticos de ordenación del territorio o intereses económicos por lo tanto esa es la posición del partido popular la hemos expresado muchas veces y yo creo que seriamente esto está muy bien para agitar

gracias otra vez presidenta muy brevemente únicamente para decirle al señor maeztu que en la mesa es que no viene al tema hablar ahora pero es que no hubo ningún veto en esto como

hay un servicio jurídico de la cámara que presenta un informe que explica por qué no se puede llevar a cabo el debate de la ilp y estaba el representante de su grupo y se lo puede contar no hubo votos es que no es por defender a los demás grupos parlamentarios pero es que ni grupo popular votó ni el grupo nacionalista votó ni el grupo socialista votó tampoco votó

tampoco hubo un informe jurídico que se puso sobre la mesa y como hay que hacer escuchar a los servicios jurídicos de la cámara porque entre otras cosas son los que más saben de leyes y punto y las normas están para cumplirlas en la cámara del parlamento vasco y en el tribunal constitucional

a mí también pero las sentencias están para cumplirlas y si el tribunal constitucional tiene jurisprudencia que ya está sobre la mesa

no le gustará pero es que está para cumplirla y lo que hoy traen aquí es ilegal

que no se puede contradecir desde una autonomía una ley que emana del estado entonces se puede poner usted como quiera le puede parecer que se protege mucho más el medio ambiente

y si no utilicemos las instituciones para cambiar las leyes porque para eso estamos los partidos políticos y no para arengar masas

utilizando mentiras y yendo a muchísimos municipios a incendiar este tema sabiendo lo que viene detrás cuando están mintiendo porque no se están haciendo cosas

los pueblos fundamentalmente de álava también de euskadi y también se están empezando aunque hablan mucho de euskal herria a recorrer algunas comunidades autónomas más allá de la muga

también le diré que los argumentos son jurídicos no excusas

y desde luego yo no soy abogado pero me intereso por cómo se llevan las cosas y qué supone sentencia jurídica ante el planteamiento de una modificación de ley

autonómica y le diré que por favor no se hagan siempre dueños de la mayoría social de este pueblo porque no habéis dejado hablar al pueblo vasco es que el pueblo vasco

y vota al señor maneiro entonces ya está bien de utilizar todos los debates que llevan detrás una pancarta normalmente suelen llevar pancartas para decir que la sociedad vasca está detrás de esa pancarta oiga que no

y parece que aquí otros muchos vascos tampoco entonces ya está bien de las mayorías sociales que representan al pueblo porque mire yo también soy vasca y ustedes no me representan en nada

podemos coincidir y seguramente en esa ponencia que gracias a su voto

en aras de no sé qué para hacernos a los demás culpables de los males sociales también medioambientales del país vasco mírese un poquito por favor su portal para empezar a darnos lecciones a los demás también de temas medioambientales

coherencia usted estuvo conmigo en el debate de la estrategia energética y se aprobó una resolución que propuso esta parlamentaria en torno a seguir estudiando e investigando las exploraciones también gasísticas por lo tanto

es absolutamente contradictoria con eso que usted aquel día votó

y seguramente la ponencia usted sabe igual que yo que esa muletilla no va a ir

respecto a este tema entonces creo que esto ha sido una utilización partidista y electoral de un tema en un momento concreto que en vez de debatir en septiembre se debate hoy

creo que el posicionamiento hubiera sido totalmente contrario por lo tanto

sí gracias presidenta buenos días a todos egun on denoi debo decir que upyd

y los propósitos planteados en esta proposición de ley de las juntas generales de álava de modificación de la ley de conservación de la naturaleza que

debatir nosotros compartimos los objetivos y los propósitos e incluso la filosofía de lo que ahí se plantea compartimos básicamente lo que se dice en la exposición de motivos y compartimos también la propuesta de modificación del apartado cuatro

diecisiete que no voy a leer porque lo conocen todos perfectamente bien respecto a las actividades mineras es obvio en nuestra opinión que estas actividades son incompatibles con la protección de los espacios naturales ya que la actividad

el territorio sobre el que incide han de pasar cientos de años para que se renaturalicen los territorios afectados y respecto

hemos debatido en esta cámara y sobre el que debatiremos en el futuro cabe decir que

la circulación intensiva de camiones y la construcción de bolsas o depósitos para las aguas de retorno contaminadas ya serían razones suficientes para oponerse a esta actividad en un espacio natural protegido

y esto sin entrar en profundidad en lo que implica la técnica del fracking

que en otros países como todos ustedes saben ha sido directamente prohibida o sobre la que se han aplicado moratorias conocen perfectamente los impactos contaminación de suelos del agua subterránea y de superficie contaminación de los acuíferos contaminación

leves movimientos sísmicos incluso contaminación atmosférica uso excesivo de agua emisiones de gases de efecto invernadero

etcétera los impactos por lo tanto de esta técnica están perfectamente contrastados y demostrados por lo tanto ya digo que compartimos los objetivos los propósitos de lo que esta esta modificación planteada propone

finalmente se ha aceptado la toma en consideración y por lo tanto nosotros trataremos de mejorar en lo que se pueda esta modificación esperamos

modificar esta misma ley en sentido contrario como aquí se ha dicho es decir para posibilitar la explotación de canteras subterráneas y en superficie

compartimos esos propósitos compartimos esos objetivos pero no hemos podido votar a favor de la toma en consideración porque efectivamente como aquí también se ha dicho existen más que dudas razonables sobre su legalidad o sobre su constitucionalidad y esto último

ha hecho imposible votar a favor de la toma en consideración de esta ley y de ahí la abstención perfectamente coherente por parte de
unión progreso y democracia muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

que este debate no es un debate técnico no es un debate sobre unas normas

se puede ver con claridad cómo planificamos un territorio y al servicio de qué ideas y qué intereses para servir a unos

los intereses monetaristas y de mercado de un lado o los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad de otros sin distinción alguna entre ellos en función del lugar en el que residan rompiendo así con la dinámica perversa de capitalización y recentralización de todos los servicios en la capital en detrimento de las comarcas en detrimento de los eskualdes guretzako

porque dichas directrices fueron diseñadas sobre una apuesta por un modelo territorial ya agotado agortuta dagoen lurralde egitura bat eredu hartuta diseinatu ziren lurralde antolamendurako

fueron pensadas y planeadas en un contexto donde el boom inmobiliario o mejor llamado burbuja inmobiliaria

asociada a dicha burbuja inmobiliaria dominaban y predominaban sobre cualquier lectura sobre el modelo territorial de futuro para la cav garai hartan

porque como décimos las directrices de ordenación del territorio y los subsiguientes planes territoriales parciales estaban y están y ahí que queramos cambiarlas

de un modelo económico neoliberal desarrollista clasificando para su transformación urbanística mucho más suelo del necesario para cubrir las necesidades reales de desarrollo y queremos modificarlas precisamente para invertir esa tendencia debemos partir de lo ya clasificado aprovechando las vacantes de suelo clasificado y priorizando en todo caso la utilización de suelos ya transformados porque no podemos obviar una preocupante realidad los niveles de ocupación de suelo en nuestra comunidad rozan el colapso

a día de hoy tenemos el índice más alto de europa de viviendas construidas y paradójicamente cada vez más gente desahuciada los polígonos periféricos de actividades económicas para grandes superficies

han aumentado en un treinta y siete por ciento lo que ha provocado entre otras cosas una mayor degradación ambiental una mayor precarización laboral que se da fundamentalmente

y un fin del pequeño comercio en las localidades que amparan

superficies pero además de eso ha logrado una mayor ineficiencia una ineficiencia inimaginada hace tiempo

se ha incrementado en un cien por ciento en los desplazamientos diarios de más de cincuenta kilómetros

beharko luke es urgente que adoptemos un cambio de orientación política en las directrices de ordenación del territorio a fin de ofrecer suelo y suelo edificable en función de las necesidades reales de la ciudadanía y no de los mercados

que eluda macroproyectos de infraestructuras urbanísticas de dudosa utilidad social pero sí alto coste se trata desde nuestro punto de vista de equilibrar el territorio con una visión de conjunto para y por euskal herria donde las actividades de la ciudadanía se equilibren en el territorio

del mismo algo que camine en la dirección de la biomímesis y no en sentido contrario en la utilización del medio natural para satisfacer las necesidades inmediatas de una sola generación integrando así la triple dimensión de la sostenibilidad la social la económica y la medioambiental eta ez da horrelakorik egin

que no le hará demasiada gracia al inventor de dicho término a joxe irazu

es precisamente la mejor manera de descapitalizar el conjunto del territorio la mejor manera de crear ciudadanos de primera y de segunda la mejor manera de hacer más insostenible nuestro modelo de sociedad y más insostenible las relaciones sociales dentro de nuestro modelo de sociedad porque genera ciudadanos de primera y de segunda categoría únicamente por el lugar en el que residan ya hay agentes sociales que definen a su modelo ese de euskal hiria

que no tiene otro objetivo y eso lo dicen ustedes quienes promovieron la modificación de las dot es decir los señores del partido socialista

un territorio competitivo para la producción en el nuevo contexto internacional de espacios económicos

de inversiones innovadoras es decir arrodillarse a los mercados

eso y no otra cosa es lo que ustedes dicen con esta frase que primen los intereses de mercado

sobre el hábitat y que prime la necesidad de responder a las necesidades

sobre las necesidades reales de nuestros ciudadanos y ciudadanas y es que sino derogamos

de las directrices de ordenación territorial con carácter urgente nos lanzaremos en caída libre hacia el colapso territorial con una mayor

artificialización del suelo construyendo cada vez más viviendas por muy necesarias que sean estas

supongo que no sin embargo las medidas que se incluyen en la revisión o modificación de las dot

por más que crear más vivienda vivienda de tres tipos

la vivienda en la que uno habite la residencial

e incluso la especulativa permitiendo que sea utilizada como fin de inversión retrotrayéndonos

del siglo pasado se entendía como una estimulante inversión que no era otra cosa que una especulación rampante pero también

únicamente señalaré un par de datos en la comunidad autónoma vasca nos aplican estas dot y donde se quiera aplicar esta modificación solo

rompiendo así y estando muy lejos por tanto de lo que la propia unión europea establece la unión europea de los veintisiete como lógico y razonable que es que un cinco coma dos por ciento

y así con ese cero coma nueve mísero que tenemos provocado por medidas territoriales que alejan a los baserritarras de cualquier estímulo

el autoabastecimiento solo alcance al cinco por ciento de las necesidades de la comunidad autónoma vasca y ser aun más dependientes de los consumos inducidos que nos llegan también a esta comunidad autónoma únicamente con subir al cinco por ciento que estima la unión europea como necesario

romperíamos con la dinámica de perdida del cuarenta por ciento de nuestros baserritarras que es lo que ha venido perdiendo en las últimas dos décadas la comunidad autónoma vasca con respecto

hacia el espejismo energético y los flujos de movilidad nuestra capacidad de autoabastecimiento

y solo nos centramos en centrales de producción de combustión de gas por formas convencionales o no convencionales como se ha debatido en el punto anterior en la cav

ha crecido un cincuenta por ciento y la movilidad un trescientos catorce por ciento

que sea equilibrado ni razonable asistir con indiferencia a esa descompensación y sin embargo seguimos hablando de más carreteras más puertos más aeropuertos

nada otra vez del compromiso de la unión europea del veinte por veinte veinte por ciento en la reducción de consumo

veinte por ciento más de apuesta en energías renovables y todo ello para el dos mil veinte nada de eso aparece inspirado en la filosofía de modificación de las directrices de ordenación de territorio

económica y a los servicios en detrimento nuevamente de los eskualdes los eskualdes

de los servicios básicos de sanidad de educación de desarrollo económico de protección social se está generando con estas medidas ciudadanos de primera y de segunda categoría

la cohesión social utilizando en todo caso a los eskualdes como depósito depósito de canteras depósito de vertederos depósito de hipotéticas incineradoras esos en todo caso son nuestros intereses la defensa de los ciudadanos y ciudadanas con independencia de donde vivan fíjense qué intereses más perversos tenemos frente a otros intereses

por desgracia nos estamos avocando en la caída libre con medidas como las que se querían implantar con el anterior gobierno en la gobernanza corporativa y en la exclusión de la participación social y esto

significa que con la pretendida y beneficiosa colaboración pública privada se conforman preferencias claras entre instituciones y ciertos sectores económicos muy peligrosos por cierto como se está demostrando y como el compañero dani maeztu ha explicado con anterioridad desde este mismo atril convivencias

orientar posteriormente e influir en último término en las decisiones que el poder público tiene que tomar y claro eso suele tener un precio o suele tener un premio no sé

sí y eso tiene que ver con la relación extraña paradójica que se da entre grandes constructoras y grandes partidos que a su vez adjudican grandes obras

para todos aquellos que hablan de regenerar la política y no me estoy refiriendo al modelo de regeneración política

porque también es peligroso el sistema de puertas giratorias que le hace a uno ser muy válido para la gobernanza

o para dirigir y ser dirigente de consejos de administración tan relevantes como el de endesa o cualquier otro que se ha señalado también por mi compañero en el punto anterior en consecuencia con ese modelo al que nos llevan prima lo monetarista y la participación social se ve como un obstáculo

irekita y por esa misma razón hemos suscrito una enmienda transaccional con el grupo nacionalistas vascos porque recoge las tres pretensiones que acabo de citar

que se retiren con carácter inmediato la modificación de las directrices de ordenación del territorio y que se revisen las directrices de ordenación de territorio atendiendo a criterios que obedecen a la realidad actual

con criterios medioambientales económicos sociales y también de perspectiva de género porque en esta cámara a veces se nos olvida que en el dos mil cinco se aprobó una ley la ley de igualdad que a todos

nos congratuló que todos jaleamos pero que luego en la aplicación práctica de la ley pocos tenemos en cuenta porque no intentamos integrar la perspectiva de igualdad la perspectiva de género

es imposible generar una verdadera dimensión de igualdad y una verdadera política de transversalidad en este tema pero en cualquier caso ya señalamos que nuestra apuesta en dicha revisión va a venir

uno el redistributivo porque creemos en la descentralización y subsidiaridad de los eskualdes y con referencia y no dependencia de las capitales en la multifuncionalidad

y en clave de proximidad porque apostamos por un territorio en clave de hábitat y no solo para producir ganar dinero y hacerlo a corto plazo en la solidaridad

porque creemos que la búsqueda de la rentabilidad en exclusiva segrega a las personas de un territorio en función de su ubicación en una capital o no en la sostenibilidad porque apostamos por la soberanía alimentaria ese término que tanta hilaridad les causaba a algunos

porque creemos en la diversidad ecológica porque creemos en la relocalización en proximidad de los servicios y en la descentralización de la producción energética todo eso

y a los intereses espurios de las cuatro manos que dirigen los mercados y sobre todo y también con la igualdad con una conciliación real de la vida laboral y familiar porque para quien no lo vea con los modelos territoriales que se están describiendo la movilidad cada vez es mayor y donde las mujeres todavía y por desgracia siguen ocupándose de la sostenibilidad de la vida a través del cuidado y atención a las personas dependientes y a los niños estamos dificultando su inserción en la vida laboral y estamos dificultando fundamentalmente su conciliación en términos de dignidad de la conciliación laboral y familiar

tal y como se indica la parte justificativa de la proposición no de ley de eh bildu en noviembre del año dos mil diez el departamento de medio ambiente planificación territorial agricultura y pesca dio inicio al procedimiento de modificación de las dot considerando que se trataba de una modificación no sustancial ya que no se pretendía cambiar radicalmente el modelo territorial establecido en las dot vigentes sino complementarlo y así fue acordado por el consejo de gobierno eso sí hay que tener en cuenta que el anterior gobierno

sino que dio continuidad a los trabajos que se habían iniciado en el año dos mil seis por el equipo de gobierno anterior

planificación territorial a la cabeza y la actual

en aquel momento viceconsejera de ordenación territorial y aguas esto es la

así los trabajos referidos a la modificación de las dot fueron avanzando

de dos mil doce se aprobó inicialmente la modificación y se sometió a información pública y audiencia del conjunto de las administraciones en este marco se

y en este periodo de información pública se presentaron un buen número de alegaciones

las presentadas por algunos ayuntamientos gobernados por bildu y también las impulsadas por un grupo denominada desazkundea los sindicatos lab ela ene y otras organizaciones sociales

de defender un modelo desarrollista y neoliberal y se planteaba reiniciar el proceso con un diagnóstico participativo etcétera

lo que pretende la proposición no de ley de eh bildu que tratamos hoy aquí que a su vez es copia de la presentada por aralar en esta cámara en junio del año dos mil doce

del año dos mil doce celebrado en bilbao los días veintiséis y veintisiete de noviembre se sometió a debate el propio concepto de euskal hiria concepto que

un concepto que parte de la consideración de que somos una ciudad región y que nuestra estrategia territorial debe basarse en la colaboración y complementariedad

las ciudades intermedias y el resto de los pueblos y núcleos de tamaño diverso que

en una visión integral del territorio y de sus infraestructuras y equipamientos

y la consideración del gas como la energía de transición en la interrelación

en la protección y revalorización de los espacios naturales agrarios y forestales así como de los paisajes en la movilidad sostenible en priorizar el reciclado de territorio el uso de los terrenos ya artificializados minimizando al máximo la necesidad de ocupar nuevos suelos en el impulso de la innovación

y muy especialmente en lo social coincido con los proponentes en que la organización y planificación territorial es necesaria

a la crisis que afecta al ámbito económico ecológico energético y político

en muchas cosas entiendo que en lo sustancial tenemos una buena organización y planificación territorial

no son algo aislado sino que forman parte de todo un sistema de planificación territorial

en la ley de ordenación del territorio que los socialistas vascos impulsamos en su día un sistema de planificación territorial que además

por los planes territoriales parciales de las quince áreas funcionales en que las

del país vasco planes territoriales parciales de los cuales once

aprobados definitivamente y el resto los cuatro restantes están elaborados pendientes de aprobación faltando la aprobación de los planes territoriales parciales de gernika markina y mungia impulsados por la diputación foral de bizkaia

promovido por la diputación foral de gipuzkoa y el de donostialdea bidasoa bajo responsabilidad del gobierno vasco además

de zonas húmedas de litoral ríos y arroyos etcétera

el plan territorial sectorial agroforestal que por fin podrá aprobarse definitivamente

entendemos que este sistema de planificación territorial puede y debe ser mejorado y complementado a través de una modificación

que incorpore al modo territorial de las directrices vigentes algunas nuevas directrices que enriquezcan lo previsto vigentes muy especialmente directrices en las que se priorice el reciclado del territorio

directrices que incorporen decididamente la movilidad sostenible directrices que permitan la incorporación de la variante paisaje en todas las políticas públicas

directrices que impulsen el desarrollo de la innovación de las tecnologías de la información y de la comunicación pero que al mismo tiempo tengan en cuenta la importancia del sector industrial y de nuestra economía

tomen en consideración la sostenibilidad en su integridad

en lo ambiental y en lo económico somos conscientes de la importancia de que

institucional y social posible pero también hay que tener en cuenta que desde el año dos mil seis se ha avanzado mucho trabajo en la modificación de las dot un trabajo que entendemos

por eso lo que proponemos los socialistas a esta cámara es que el gobierno vasco

para su complementación y mejora y que en este marco

y participación política y social con el objeto de obtener el mayor consenso político institucional y social posible consenso sobre el modelo territorial de euskadi y sobre las estrategias territoriales precisas para su consecución entendemos que se ha hecho un trabajo muy importante por el anterior gobierno y también por el que le precedió entendemos que como consecuencia de ese trabajo estamos en condiciones de enriqueciendo en este proceso de aprobación definitiva

tener unas directrices que permitan

que necesitan para poder ser una herramienta

y el dejar encima de la mesa todo esto el suspender la modificación

un proceso que seguramente no nos llevará a ningún sitio espero no equivocarme pero

quiero ser mal agorero pero la sensación que tengo es que

nos va a llevar a consolidar lo que en estos momentos tenemos lo vigente en estos momentos que ciertamente necesita de la modificación y en eso se ha trabajado

y que la alternativa de dejar esto encima de la mesa nos llevará probablemente a un callejón sin salida

que yo creo que han servido de modelo en el estado inclusive fuera del ámbito estatal pero

eran unas buenas herramientas para el momento en el que fueron elaboradas y aprobadas no obstante nuestro grupo

la iniciativa que ahora debatimos debe ser apoyada tanto por razones de oportunidad como por razones de legalidad en la medida en que ambas pueden separarse cuestión harto difícil muchas veces

recurrimos a dos conceptos que se utilizan en la legislación de evaluación del territorio que son la modificación y la revisión de los instrumentos

un sentido amplio pueden ser equiparados en la medida en que en los dos casos se produce una alteración de la planificación territorial

en esta ley tenemos si me permiten ordenados de mayor a menor grado de intervención según el contenido de las alteraciones las siguientes cuatro clases de modificaciones tenemos en primer lugar una revisión lo que podemos llamar una revisión ordinaria que es la que se produce cuando ha trascurrido el plazo su aprobación en este caso eran ocho años que se señalaban desde de aprobación y como

hace ya dieciséis años que se aprobaron las mismas la segunda sería una revisión extraordinaria cuando se produzcan determinadas circunstancias que hacen procedente su propia revisión como son las relativas a las hipótesis de alteración de la población que creo que estamos en ese momento

huelga a hablar de ellos sobre la importancia de eso o bien el mercado de viviendas son tres elementos que desde luego para nada coinciden con lo que ocurría en los años mil novecientos ochenta mila bederatziehun eta

el modelo de planeamiento que fue elegido en su momento y fue aprobado y finalmente una modificación no sustancial o simple que no afecta como digo a los elementos sustanciales y que tiene un carácter residual

uno muy concreto y específico con abundantes trámites que quizás igual usted por eso decía que

le veía un poco negativo respecto a que prospere pero la ley está para cumplirla señor arriola

y la cuarta de esta la modificación simple le es aplicable un procedimiento específico abreviado y muy sencillo

es preciso llamar la atención sobre el hecho de que el gobierno ya en el año dos mil

transcurridos por tanto nueve años desde su aprobación ya el gobierno inició los trabajos

los mecanismos para la revisión del modelo territorial el expediente iniciado por el gobierno en el año dos mil diez que motiva la iniciativa que ahora

una incorrección importante incorrección que consiste en tramitar

algo que supone una modificación sustancial señor arriola se pretende de hecho o se pretendía producir

sin las garantías procedimentales y de participación podíamos decir

en vez de utilizar el camino debido para tramitación del procedimiento ha utilizado un atajo pero sobre todo

documento determinado porque

con este expediente sobre una estructura general contenida en las directrices de los años mil novecientos ochenta

se introducen elementos propios de otro sistema de un sistema que corresponde posiblemente a problemas

quiero llamar la atención sobre el hecho de que el expediente contiene varios aspectos también como digo que a nuestro juicio sirven para calificar

el relativo al medio físico y otro referido a la cuantificación residencial este último

por lo que respecta al modelo físico en el que los valores ambientales son elementos sustanciales del modelo y en eso creo que coincidiremos todos

el suelo que tenía consideración de espacio protegido apenas alcanzaba el cinco por ciento de la superficie de la comunidad autónoma ahora con esta modificación alcanza el veinticinco

se incorpora a una categoría de suelo excluida para el desarrollo de infraestructuras actividades económicas

interesante que es el de la llamada senda del mar el valor del litoral como elemento para lograr un territorio más atractivo y no es que nos parezca mal esta

es más estamos de acuerdo con ella lo que décimos es que este hecho debe ser valorado debe ser contrastado con otras administraciones y por supuesto con la participación de la ciudadanía en un determinado y concreto procedimiento y esto no es lo que ha ocurrido en el caso por otro lado por lo que se refiere a la actualización del procedimiento para la cuantificación residencial era y es una de estas pocas cuestiones

ahora se nos cambia el modelo de cálculo se establecen precisiones que antes no existían

del gobierno un treinta y tres por ciento menos en el número de viviendas que se permiten en cada municipio

por estas razones que entendemos que son sustanciales nuestro grupo

y que se retomen los trabajos de revisión de las dot con inclusión de varios aspectos que no voy a repetir porque ya se han comentado pero sí uno que nos parece de interés que es el relativo a las cuestiones del paisaje que

preocupación social por este problema pero ahora debe ser incorporado

en estas directrices y animo al resto de grupos a incluido al señor arriola reconociéndole efectivamente que en las directrices de ordenación del territorio nos pusimos de acuerdo una

conseguiremos en el proceso de revisión que ahora se avecina seguramente yo soy optimista y quiero pensar que en esta legislatura seremos capaces de entre todos alcanzar algún acuerdo para tener unas nuevas directrices

muchas gracias señora presidenta la verdad que es sorprendente el debate que yo

no sabía la capacidad que tenían las dot de producir tantos males en todos los aspectos

en este país pero bueno si el señor proponente lo considera así será que es así que las el gran problema que teníamos en este país

hablamos de que no hay igualdad de género que no hay conciliación de la vida familiar y laboral por culpa de las dot del no sé qué sistema neoliberal que si las

que por lo visto es la panacea para solucionar el paro en este país yo le animo

a que vaya diciéndole a la gente que se dedique a cultivar las huertas que es lo que les va a sacar del paro y con lo cual van a mejorar

y por supuesto hay que hablar de autosuficiencia alimentaria y de todas estas cosas que quedan muy bien pero bueno

está haciendo hoy el papel que está haciendo pero el que me tiene sorprendido es el gobierno vasco y digo que me tiene sorprendido porque está claro lo que planteaba eh bildu que es lo que han planteado siempre que había que quitar las dot que existen porque siempre han estado en contra

que estaba en su día a favor ahora esté también en contra y sean nefastas y malísimas y haya que cambiarla radicalmente esa es la propuesta que venía de eh bildu estaba la propuesta del partido socialista que es la que

bastante tiempo procede renovar esto que yo creo que en eso por lo menos estaremos todos de acuerdo y luego estaba la propuesta del gobierno y la propuesta del gobierno que ha traído esta cámara es que las

e impulsar los planes parciales esa es su enmienda que faltan por desarrollar y hete aquí que de la noche a la mañana el partido del gobierno

se suma a la iniciativa original es decir las dot hay que cargárselas

y hay que suspender que era en lo que coincidían inicialmente los dos el procedimiento iniciado

han pasado ya unos cuantos años desde que se aprobaron y todos estaremos de acuerdo en eso

lo que me sorprende del partido nacionalista vasco y de este gobierno es que

y que hay que suspender cualquier tramitación de modificación ahora nos diga todo lo contrario

le voy a leer le voy a leer su enmienda su enmienda que literalmente dice suspender el procedimiento de modificación

y punto dos agilizar la tramitación de los planes territoriales parciales pendientes de aprobación definitiva es decir desarrollar lo que falta de desarrollar

pelín obsoletas por lo menos en alguna parte sobre todo cuando su propio gobierno ya empezó como ustedes mismos han dicho en el dos mil seis la reforma de esas dot porque había pasado mucho tiempo

no sabemos si está desnortado no es serio o lo que está haciendo es voy a suspender el procedimiento de tramitación vamos a revisar

y al final como esto es una competencia del gobierno y esto se aprueba por decreto del gobierno

si a usted no le gusta parte del expediente que se está tramitando en estos momentos de la modificación en el gobierno están ustedes

incluyen lo que consideran que falta lo que no les gusta lo quitan porque ustedes están en el gobierno y las dot se aprueban por decreto del gobierno se aprueban por decreto del gobierno

al procedimiento de modificación iniciado es que no le gusta como se estaba llevando a cabo oiga modifíquelo usted

pero ustedes qué están planteando aquí ahora están planteando no no vamos a dar carpetazo a la modificación inicial y

cómo hacemos y cómo no hacemos yo no sé si les han engañado a estos señores o no les han engañado diciendo

nos ponemos de acuerdo con ellos tenemos un mandato del parlamento que nos dice se suspende la modificación que se está tramitando ahora y luego como esto es una cosa del gobierno ya haremos

que era no modificar nada entonces le digo que estoy un tanto perplejo con su

pero más perplejo me deja la transacción que han firmado porque en el fondo dice lo contrario de su enmienda pero como esta es una competencia del gobierno a lo mejor lo que se llevar a efecto su enmienda es decir no revisamos nada de las dot

hace lo que quiere nosotros visto lo que se ha planteado es evidente que nos parece más razonable la enmienda del partido socialista y es que se prosiga la modificación y la adecuación de las dot a los tiempos en los que vivimos y evidentemente que tienen que tener una finalidad

que es por lo menos tener en cuenta el nivel de paro actual que tenemos en la comunidad autónoma y que por lo menos pongan bases

nosotros no pensamos que sea que cultivando huertas sea como vayamos a resolver el paro muchas gracias

seré breve al señor damborenea decirle únicamente dos cuestiones

que no hay una novedad en la postura que euskal herria bildu trae a debate con esta cuestión por lo tanto mantiene un hilo de coherencia con lo que hemos venido señalando desde muchos campos

pero sí decirle dos elementos yo no le subestimo y le tengo una cierta consideración como para pensar que usted

y relativice como lo ha hecho en su intervención sobre la

el cómo organizamos la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas tiene el cómo distribuimos el territorio y en qué asignamos el territorio para qué tipo de cosas si para macroinfraestructuras como grandes carreteras o para otro tipo de cuestiones no le tengo tan poca consideración como para pensar que de esto no sabe nada y que no sabe que aquí hay un debate político

y nosotros no hemos dicho que esto arregle la igualdad de género lo que hemos dicho que por respeto institucional a lo que este parlamento aprobó en el dos mil cinco

esa misma ley en su artículo diecinueve y creo que en el cuarenta y tres establecía

todo proyecto normativo jurídico debiera atender al criterio de género para poder avanzar hacia la igualdad efectiva y real y ni siquiera esto se cumplía en la modificación de las normativas

de los planeamientos urbanísticos que se hace en nuestro territorio también se consigue facilitar o dificultar la conciliación de la vida

los que puedan estar escuchando en algún momento este debate que todavía hoy la mayoría del peso de la atención a cuidados a personas dependientes y a niños recaen en las mujeres y que si a estas les generamos un modelo territorial donde los desplazamientos

andar o recorrer más kilómetros para poder cubrir todas las necesidades lo que estamos haciendo es dificultarle las propias condiciones de desarrollo en este caso de las mujeres eso es lo que he señalado y creo que no es tan complicado entender y sí le diré una cosa porque no perderé demasiado tiempo yo no he dicho que la fuente principal de eh bildu para la generación de empleo sea el sector agropecuario

decayendo hasta morir porque medidas como las de las dot y otras políticas lo que hacen es minimizar

lo único que conseguimos es ser dependientes también en el terreno de lo alimentario

favorecemos y potenciamos lo que podríamos hacer nosotros y nosotras mismas sí señalo en todo caso que mejor y seguramente cualquier ciudadano como usted decía el que me dirija aceptará de mejor grado poder cultivar una huerta que esperar de manera indubitada y casi eterna las listas de lanbide a que les encuentre un salario de miseria en el caso que los encuentren

hasta en ese caso sería más positivo lo que planteamos pero ya le he dicho antes que esto tiene más que ver con la soberanía alimentaría y esto convencido que eh bildu dará motivos para que de este tema también hablemos en esta cámara en otras ocasiones respecto a lo que ha dicho el representante del partido socialista el señor arriola únicamente comentar tres cuestiones

queremos ir mucho más allá que la mera presentación de alegaciones que es lo que ciertamente se hizo

pero que no es del todo suficiente que no permite y habilita una participación ciudadana activa y sobre todo vinculante en la toma de decisiones

de los territorios y de las ciudades y de los pueblos que engloban a euskal herria porque creemos que ahí una distinción que genera como le he dicho antes ciudadanos de primera y de segunda nos ha hablado de las voluntades de la modificación sustancial de las directrices de ordenación del territorio y nos ha hablado del impulso de las energías renovables y con modelo de transición con el gas la realidad es que en los presupuestos que se presentaban cincuenta millónes de euros se llevaba el análisis y estudio de los proyectos extractivos de gas como el fracking y cinco coma cinco millónes

eso son números objetivos no son interpretaciones ni subjetividades con las que yo acompañe mi intervención son los números objetivos de un presupuesto que era suyo que no era nuestro se habla también de una buena organización territorial una organización territorial es buena cuando permite que siga aumentando la huella ecológica

cuando llevamos hacia el colapso de ocupación de suelo en realidades superiores al ochenta por ciento como el gran bilbao y como donostialdea es buena cuando la segregación social aumenta es buena cuando el cien por ciento como le decía antes los desplazamientos diarios aumenta un cien por ciento los desplazamientos diarios en distancias superiores a cincuenta kilómetros no hemos quedado aquí en esta tribuna en muchas ocasiones

que los puedan casi determinar por su cercanía y lo que hacemos es en este caso ampliarlos por fortuna aquí y eso es cierto no hay aeropuertos tan baldíos y tan inútiles como el de castellón pero en cualquier caso sí hay infraestructuras generadas y pensadas al servicio

ningún interés social y lo que es peor han hipotecado gran parte del suelo que necesitamos

efectivamente parece que en base a intereses diversos confluye en un voto único
por la explicación que se ha dado en esta tribuna por los diversos portavoces

está claro cuáles son las argumentaciones que emplea el portavoz de

suspensión de la modificación de las dot y también el portavoz del partido nacionalista vasco como nos ha aclarado cuáles son sus razones para apoyar

que no tiene absolutamente nada que ver con las que se planteaba a parte

que el status quo que tenemos en estos momentos vigente se mantiene y que además esto se hace un brindis al sol

para que podamos concluir con una modificación sustancial de las actuales

mal agorero pero me imagino que pasará la legislatura y no tendremos

aprobada para euskadi y lo que tendremos es

adaptadas a los nuevos tiempos a las nuevas realidades que

economía del país es verdad que

y a la dedicación de los trabajadores vascos porcentualmente a lo que es el sector primario que si somos el cero coma nueve que deberíamos ser el cinco probablemente

estas cosas incluso también la autosuficiencia energética se arreglarían sustancialmente si en vez de dos millónes de habitantes fuéramos medio millón igual

que ustedes predican van en esa línea de que seamos un segundo vial desde el punto de vista económico no seamos sostenibles de ninguna forma

desde el punto de vista de la dedicación de nuestra gente a lo que es el sector primario y seremos mucho más autosuficientes energéticamente pero seremos

y un país en el que habremos perdido todas las oportunidades de futuro y le decía

esta enmienda transaccional que va a salir aprobada en esta cámara pues claramente responden a

modificación sustancial es una especie de atajo lo que está haciendo este gobierno bueno este gobierno pasado supongo que se somete

que son muy exhaustivos usted conoce y que lógicamente si ha llegado hasta donde ha llegado no es porque hubiera unos informes jurídicos que dijeran que el procedimiento

estuviese viciado desde el punto de vista de la legalidad pero al final las razones son las que usted

es que se pasa de un suelo protegido del cinco por ciento a un veinticinco por ciento

querrá que sea de setenta y cinco no sé se pasa del cinco al veinticinco y claro además cambia el procedimiento de cuantificación residencial y eso supone que el modelo de cálculo trae como consecuencia que

supongo que ahí se ve claramente que las razones de uno y de otros son sustancialmente distintas pero lo que ocurre en última instancia es que concluyendo

la realidad es que las dot no se modifican se quedan como están se van a seguir aplicando

y lo que hacen ustedes es un brindis al sol que

seguramente no lo que va a suponer es que estemos de alguna forma blindando la vigencia actual de las dot en su redacción

actual de ahora y hacia el futuro no sé por cuánto tiempo supongo que por mucho y

tribuna y en esta cámara dentro de un tiempo de ver qué pasa de aquella revisión que se comprometieron

eskerrik asko presidenta andrea señor damborenea creo que usted

pero en absoluto la suspensión del procedimiento nos lleva al momento cero de planeamiento es decir año dos mil diez esto no quiere decir que no haya ni directrices ni que se vaya al carajo los trabajos realizados de revisión no

al año dos mil diez en los que los señores del partido socialista iniciaban el procedimiento de modificación

respecto a las cuestiones de fondo de por qué entendemos que son

cuantificación residencial nosotros seguramente estamos de acuerdo con el tema de fondo

queremos que haya unas buenas directrices hay que ser absolutamente escrupulosos con el procedimiento no podemos trabajar cuatro o cinco años y que tengamos el culo al aire en pleno procedimiento con perdón de la expresión que alguien cualquiera que las recurra

eso es lo que nosotros desde luego no estamos por la labor como decía

y lo que no podemos es insisto es introducir cuestiones importantes como esta que le comento

algunas actuaciones de estas similares y nos han generado enormes problemas como es todo lo relativo a los sistemas de protección de la red natura dos mil

políticos ilegales impresionante y lo que no queremos es que eso vuelva a ocurrir

respecto a la preocupación del señor damborenea y por eso digo que yo creo que no me ha escuchado

planes territoriales parciales se siguen desarrollando en la aplicación

acordemos aquí lo que acordemos o sea las directrices tienen vigencia indefinida y a pesar de que están creadas para ocho años sin embargo y transcurrido ese tiempo no es que queden derogadas es que siguen teniendo vigencia hasta que no se

desde el año dos mil seis en que se iniciaron los trabajos de revisión señor damborenea se

y no ha pasado absolutamente nada o sea no venga usted aquí diciendo que esto supone que los

de una importancia grandísima como es el de donostialdea y en cualquier caso

arriola como para el señor damborenea les invito a que en la comparecencia con la consejera la semana que viene

sobre lo que este gobierno piensa hacer respecto a las directrices de ordenación del territorio

en esos bancos se sientan responsables directos del urbanismo de esta comunidad autónoma desde hace muchos años con responsabilidades de gobierno y de apoyo a leyes del suelo vigentes en este país ahora me va a decir usted o me va a explicar usted

las dos son muy importantes pero la ley del suelo suya no oigan y eusko alkartasuna ni urbanismo en esta comunidad autónoma

ustedes son responsables de lo que tenemos hoy vigente en esta materia en esta comunidad autónoma los que se sientan en esa bancada

eso porque entonces serán ustedes responsables de la desigualdad de género de los problemas de compatibilidad de la vida familiar y laboral yo no sé si usted ahora está muy preocupado porque las mujeres tardan más tiempo en llegar a los sitios

claro a lo mejor y mire yo de la autosuficiencia alimentaria de la autosuficiencia energética de estas cosas solo hablan demagogos

no sé en algún alimento en alguna producción pero desde luego y evidentemente y si usted conociera algo nuestro suelo sabría que es imposible ser autosuficiente

y al representante del partido nacionalista vasco vamos a ver me dice que le pregunte a la consejera las intenciones pero si yo las intenciones de este gobierno ya las he visto se paraliza la modificación que se está iniciando como usted dice

a aquel momento inicial y ya veremos lo que hacemos nosotros lo que les estamos diciendo es que no entendemos por qué este gobierno que tiene competencias si hay algo que no le gusta del procedimiento inicial lo cambia porque lo puede hacer que quiere ir más para aquí puede ir más para aquí que quiere ir más para aquí puede venir más para aquí

es que sabiendo que ustedes plantean absolutamente lo contrario que estos señores y estos señores lo contrario de lo que ustedes plantean se pongan de acuerdo

la situación es decir en vez de aprovechar un procedimiento que ya está en marcha decidan darle carpetazo y nos volvemos al dos mil seis

digo yo por comentar esto de la urgencia de la modificación de una normativa que lleva ya doce años o más y que encima además

faltan por desarrollar planes territoriales parciales pero faltan por desarrollarlos porque los responsables del gobierno en los últimos dieciocho años no los han desarrollado y esos responsables del gobierno se sientan ahí aquí

es no hacer nada eso es lo que están proponiendo y me está diciendo que le pregunte a la señora consejera qué intenciones tiene me han quedado claras

presidente andrea lehendakari señorías egun on denoi el grupo socialista presenta a debate en este pleno una iniciativa en apoyo

el pasado tres de diciembre y con motivo de la celebración del día internacional de las personas con discapacidad

bajo el mismo lema sos discapacidad derechos inclusión y bienestar a salvo para lanzar

ante el más evidente peligro de extinción de los derechos alcanzados por el colectivo de discapacidad en el país vasco y según la última encuesta sobre discapacidad autonomía personal y situaciones de dependencia existen

o limitación si son menores de seis años que en términos relativos supone un ocho coma uno por ciento del total de la población de ellas

un cuatro coma tres sobre el total de la comunidad especialmente dramáticos son los recortes en la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que está el gobierno de españa en los últimos doce meses ha puesto en marcha un proceso de desmantelación del sistema modificando la ley por la puerta de atrás y sin dialogar con nadie ya no se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios los recortes en el presupuesto se llevan a cabo en base a los fallecimientos

dos años y medio se recortan prestaciones un quince por ciento y en el presupuesto ochocientos cincuenta millónes de euros anuales el gobierno de españa lo que ha hecho es sacar a los beneficiarios de prestaciones en espera del sistema de atención retrasando su entrada hasta el dos mil catorce y sacando también

del grado otorgado ilustra lo que estoy contando el actual modelo de financiación según datos de presupuestos liquidados del ministerio de hacienda en dos mil nueve el estado asumía el treinta y nueve por ciento del coste del sistema de atención a la dependencia

se ha reducido prácticamente a la mitad con un veintiuno coma cuatro por ciento además los resultados publicados recientemente por el observatorio estatal de la dependencia

de un retroceso sino de una derogación

de la ley de dependencia y de falseamiento de los datos la nueva reforma de la ley de bases de régimen local puede acabar con la base de este derecho adquirido los socialistas vamos a estar muy pendientes de la próxima reforma del gobierno de españa de la ley de bases de régimen local porque afectará a los servicios mínimos de dependencia con la excusa de la crisis se está buscando un cambio de modelo social

define los servicios sociales como un derecho de la ciudadanía que se asiente en las obligaciones mínimas de los ayuntamientos ahora se plantea cambiar estos mínimos lo que supondría minar la base de la prestación los socialistas entendemos que la atención a la dependencia no se puede perder por ser un derecho subjetivo recurrible por estar respaldado por una ley estatal pero si se recorta la base la red que asienta la ley básica

económica que afecta a toda la sociedad no puede servir de pretexto para reducir los derechos sociales ni los recursos de apoyo que precisan ahora más que nunca los colectivos

cuando hay que hacer mayores esfuerzos apostando por garantizar unos servicios públicos que faciliten los apoyos y recursos que deben recibir

para asegurar el proceso de inclusión en la comunidad y un nivel de vida digno el último informe sobre la aplicación

de catorce de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en el país vasco elaborado por el ararteko refleja que los recortes derivados de la crisis están afectando a las políticas sociales además

como un colectivo extremadamente vulnerable esta vulnerabilidad

real de sus derechos por eso indica que es imprescindible que las medidas protectoras específicas impulsada por las administraciones públicas vascas tengan un efecto favorable en el ejercicio de tales derechos en el respeto de la dignidad de estas personas y en su calidad de vida

la promoción de la autonomía personal y la protección de las personas en situación de dependencia han de ser una prioridad de las administraciones públicas vascas

y en situación de dependencia juega en nuestra comunidad autónoma un papel decisivo en la intención y los servicios ofrecidos a estas personas

institucional que se dé a estas entidades por todo lo expuesto hemos percibido en este sentido una buena oportunidad en la presentación de esta iniciativa que finalmente

y con eh bildu la enmienda transaccional recoge en primer lugar que el parlamento vasco hace suyas las reivindicaciones manifestadas por el colectivo de personas con discapacidad y sus familias

que ponen en peligro los derechos adquiridos en los últimos tiempos en el segundo punto

a adoptar las medidas necesarias para garantizar a todas las personas con discapacidad el derecho al desarrollo de la vida independiente

su proceso de inclusión en la comunidad y un nivel de vida digno en tercer punto el parlamento vasco insta al gobierno vasco y al resto de instituciones vascas competentes a dar los pasos necesarios para la conformación de un sistema vasco público e integral de protección que incluya la gestión completa de los servicios sociales

a asegurar la continuidad de los programas y servicios consolidados durante mucho tiempo que están llevando a cabo las organizaciones sociales del tercer sector

afectados por una discapacidad y a seguir trabajando en políticas de apoyo a la discapacidad contando con la participación cómo no de las asociaciones y entidades sociales

insta al gobierno vasco a que en el seno del órgano interinstitucional de los servicios sociales se

y la coordinación interinstitucional entre las administraciones públicas vascas en materia de los servicios sociales

unidad eficacia y eficiencia en el funcionamiento del sistema vasco de servicios sociales y un desarrollo coherente y armónico del conjunto de prestaciones y servicios en todo el territorio autonómico asimismo habrá de orientar sus actuaciones al logro de tal propósito con la participación e implicación de las administraciones concernidas

una financiación suficiente para ello para acabar señorías subrayar tres cuestiones que considero importantes primero remarcar el tremendo impacto que el fenómeno de la dependencia tiene entre las mujeres es por ello necesario tener esto en cuenta al trazar las políticas públicas de promoción de la autonomía y atención a la situación de dependencia resaltar la importancia de garantizar la equidad territorial en el ejercicio normalizado de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias con independencia

reflejar que el despliegue y el desarrollo de la ley doce barra dos mil ocho de cinco de diciembre de servicios sociales debe ser coherente con el desarrollo y aplicación de la ley de la autonomía personal y atención a las personas dependientes

para fijar la posición en relación con la proposición no de ley que presentó el grupo socialista de apoyo a las reivindicaciones de las personas con discapacidad

se menciona la marcha en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias

el respeto más absoluto a sus reivindicaciones y compartimos muchos de los lemas y la preocupación de un sector que está viviendo una situación muy complicada fruto de la crisis económica y las políticas del partido socialista

y que el gobierno de españa junto con el esfuerzo de todos los españoles está tratando de remediar

su justificación el gobierno de españa está haciendo brutales recortes presupuestarios que suponen de facto el desmantelamiento de la ley de dependencia señora sarasua

y que para sacarle de su error le voy a dar algunos datos objetivos el partido socialista puso en marcha la ley de dependencia que tenía desde el punto de vista teórico un diseño atractivo pero que en la realidad no ha cumplido las expectativas y ha generado

con una financiación aleatoria y discrecional en función del grado de simpatía con la comunidad autónoma en cuestión el ministerio de sanidad y servicios sociales en este momento está dedicando a la dependencia el setenta y cinco por ciento de su presupuesto el gobierno socialista dedicaba el cincuenta y seis por ciento y si quiere hablar de recortes vamos a hablar de recortes quiero recordarles que el partido socialista tomó dos decisiones contundentes y que han generado

eliminó la retroactividad al reconocimiento de derechos para todos los dependientes con lo cual deja de tenerse en cuenta la fecha en que se solicita y solo se reconoce la fecha en que se resuelve la solicitud y teniendo en cuenta la demora que ha habido a la hora de resolver las solicitudes

discapacidad había decía usted

por el decreto que entró en vigor en febrero del dos mil doce pero que el gobierno

y que está provocando bajadas importantes en grado y nivel por lo tanto bajadas importantes en las prestaciones de las personas perceptoras como discapacitadas señora sarasua en los presupuestos del año dos mil once año en el que según la ley de dependencia entran a recibir prestaciones las personas valoradas en grado uno

menos cantidad que en el año dos mil diez para la dependencia

ha provocado una gran acumulación de impagados que se han acumulado a impagados del año dos mil diez dos mil nueve y dos mil ocho señora sarasua estos son datos reales y son recortes recortes contantes y sonantes pero le voy a dar más datos

en su justificación dice que se están rebajando las prestaciones económicas a los cuidadores familiares de las personas con discapacidad pues mire el gobierno

de las personas con ayuda a las personas dependientes y el gobierno del señor rajoy ha tenido que aportarlos vía presupuestos en el ejercicio dos mil trece mil millónes de euros señora sarasua

dígame señora sarasua cuántos empleos ha creado lanbide para personas con discapacidad

varios aspectos primero importantes deficiencias en el procedimiento de reconocimiento del derecho a ser persona dependiente criterios diversos según comunidades en cuanto a plazos o reconocimiento o la adjudicación de la prestación o en el tiempo que se tarda en concederse y en la cuantía que se concede se vulnera el derecho

autonomía personal y a la atención por dependencia la lista de espera a treinta y uno de diciembre de dos mil diez

personas personas que tenían reconocida la dependencia pero que no cobraban la prestación

esto supone el veinticinco coma sesenta y ocho por ciento del total de personas con este derecho la lista de espera a treinta y uno

casi un veintinueve por ciento del total es decir la lista de espera aumentó en el año dos mil once

doscientos treinta millónes de euros a treinta y uno de diciembre del dos mil doce esa lista de espera se ha reducido

seis puntos el porcentaje y el gobierno del señor rajoy ha aumentado la financiación en ciento veintidós millónes de euros ciento veintidós millónes de euros

sobre la información del sistema de dependencia el tribunal de cuentas critica la falta de homogeneidad y precisa primero

segundo se contabilizaban personas fallecidas tercero expedientes duplicados retrasos en la depuración de datos esto ha provocado que se computaran como usuarios personas que no lo eran durante el periodo dos mil siete dos mil once veintinueve mil ciento sesenta y nueve fallecidos seguían considerados como beneficiarios de la prestación por dependencia esto ha supuesto un gasto de ciento cuarenta millónes de euros dinero que iba a las comunidades autónomas

estando fallecidos andalucía es la comunidad que más fallecidos computó

veinticuatro millónes de euros que nadie sabe donde fueron o algunos igual sí señora sarasua andalucía tiene una deuda acumulada con organizaciones sociales

por ejemplo y que ha tenido que hacer el gobierno de españa para estas deudas pues ha destinado trescientos cuarenta millónes de euros

facturas pendientes de proveedores de conciertos sociales además ha destinado en el año dos mil doce

a la dependencia a favor de las personas dependientes por eso señora sarasua le digo que desde el grupo popular compartimos plenamente la preocupación por la situación que se está atravesando la discapacidad en españa y el gobierno de españa y los españoles

importantísimo para tratar de corregir estos desmanes señora sarasua además de criticar al gobierno de españa en su iniciativa propone que el gobierno vasco

los recursos sociales y superar los desequilibrios territoriales en materia de servicios sociales la verdad es que no han sido nada originales en su iniciativa

en esta cámara y por cierto fue rechazada señora sarasua ustedes

todos los problemas que la gestión de los servicios sociales planteaban en nuestra comunidad han estado ustedes tres años y siete meses en el gobierno

de hace doce años el cuatro de diciembre sin haber salido aún del gobierno presentan esta iniciativa oiga perdone ustedes son torpes

mejorables seguro claro que sí es un área sensible interminable aquí no se han aplicado recortes y las instituciones responsables están haciendo un esfuerzo importantísimo para mantener el mismo nivel de prestaciones que años anteriores

en los dependientes de grados tres la protección económica de servicio es de mil euros por ejemplo en araba cuando en el resto de españa es de setecientos quince euros

euros por persona en el resto de españa trescientos ochenta y siete la aportación siempre es superior al resto de españa y hace

pero en cualquier caso no consideramos oportuno que esto se corrija con la creación de un fondo de manera

o no ha considerado necesario implantar determinados servicios ahora le pongamos en bandeja de plata una cantidad para mantener ese equilibrio al que usted hace

una política en cualquier caso un tanto extraña señora sarasua les dimos la oportunidad de gobernar han estado en el gobierno

no lo han hecho pues ahora lo harán otros ustedes no perdieron la oportunidad

de la enmienda transaccional que se ha elaborado y vamos a votar a favor

que la compartimos plenamente pero tengo que decirle que la enmienda que ustedes han firmado no tiene nada que ver con el original lo que usted hizo

colgarse de la percha de la dependencia para venir a esta tribuna